muchas gracias señora presidenta por recordar nosotros el otro día interpelábamos al lehendakari a cuenta de una sentencia de la unión europea

que lo que nos hacía era perder veintisiete millónes de euros de fondos feder hace ya unos cuantos años la verdad es que nosotros pensábamos que el lehendakari y el actual gobierno por ende nos iba a responder que efectivamente y evidentemente ellos pensaban cumplir toda la normativa europea y que por lo tanto

plantear una moción en este sentido pero sí que nos sorprendió la respuesta del lehendakari no por respuesta suya sino

hasta la fecha y me voy a explicar esos fondos europeos no se perdieron porque fueran ilegales la forma de contratación que la legislación española la permitía

ser beneficiario de los fondos feder entonces el señor lehendakari nos dijo que fue otra brillante aportación del gobierno de rodríguez zapatero

que en el año dos mil siete con la circular uno barra dos mil siete

pues no se certificaran a la comisión es decir en vez de esperar a que la comisión nos diga

estos fondos que usted aspiraba a ellos no los va a recibir porque no cumplen los requisitos ya directamente renunciamos a ellos porque no nos adaptamos a la legislación y a los requisitos que exige la unión europea

de que solo en ese año perdimos veintisiete millónes de euros podemos estar hablando que en seis años por renuncia expresa no solo ya de los gobiernos vascos anteriores sino prácticamente del propio gobierno de españa en su momento y si los demás hicieron caso a esa instrucción

pero treinta millónes al año por seis son unos ciento cincuenta millónes de euros al año

la legislación española y la vasca en materia de contratación pero cumplir esa legislación no impide en ningún caso además cumplir los requisitos nuevos o que puede imponer la unión europea que sean distintos de la legislación específica del país miembro

es por lo que nosotros hemos planteado esta moción

voy a ser muy breve y no me voy a especificar mucho porque nosotros lo que entendemos es que no hay que hacer

es decir como si hacemos estos modificados de contratos si hacemos estos contratos complementarios

no hacer esos contratos complementarios no hacer esos modificados

que este gobierno que empiece ahora esta nueva andadura y esta nueva legislatura no renuncie de entrada a recibir esos fondos sino que intente aspirar a obtenerlos todos cumpliendo no solo la normativa

sino también las exigencias y requisitos que plantea la unión europea

al gobierno vasco es un gobierno vasco que empieza ahora la andadura de la legislatura y

para despilfarrar ningún euro al que podamos acudir y beneficiarnos de ellos más cuando estamos hablando básicamente de inversiones que lo que hacen es crear empleo estamos de acuerdo con la enmienda del partido socialista en el sentido

tiene que adecuarse y adaptarse a cumplir la normativa europea porque si alguna falla no llegaríamos a poder adquirir esos fondos

en el sentido que los nuevos requisitos y nuevas exigencias que está planteando la unión europea también hay que cumplirlas y por lo tanto hemos hecho una enmienda de transacción que yo creo que recoge más o menos lo que estábamos planteando todos y

que tienen capacidad de contratar se adecuen a la normativa

aunque no sea obligatorio porque si queremos aspirar a esos fondos que hoy nos faltan pues es la mejor manera de conseguirlo y una de las formas de poder tener medidas que sí van en la dirección de crear empleo y favorecer el país nada más y muchas gracias

egun on guztioi como ya ha manifestado el proponente hay transaccional entre el grupo nacionalistas vascos el grupo proponente y el grupo socialista en torno a esta cuestión yo creo que todos compartimos el fondo y la forma y yo voy a tratar de explicar un poco cuál es la posición de mi grupo y por qué hemos firmado esta enmienda transaccional y el porqué de nuestra enmienda las normas que regulan los fondos europeos como saben ustedes condicionan su percepción a que los poderes adjudicadores que son todas aquellas entidades sometidas a las directivas sobre contratación que financian con ello sus contratos

en nuestro caso son la sucesivas leyes de contratos las cuales no siempre hay que decirlo

y entre esos aspectos por los cuales la comisión europea ha incidido en diversas ocasiones

el señor damborenea la omisión del correspondiente procedimiento de licitación en especial la publicidad europea por entender que la entidad beneficiaría

y hay que tener en cuenta también que en parte esta infracción es imputable al propio legislador que hasta la ley treinta barra dos mil siete que no entró en vigor hasta el año dos mil ocho

adecuadamente la transposición de esta cuestión y además hay que decirlo también que hay muchas sociedades y fundaciones del sector público que les ha costado mucho entrar en la cultura de la ley de contratos

trataban de eludir la ley de contratos públicos pero hay también que decir y hay que ser justos

ese problema es cada vez más marginal el fraccionamiento del objeto de los contratos es otra de las cuestiones en las que ha incidido la comisión europea

la necesidad inicial o por no responder a imprevistos criterios de adjudicación discriminatorios

otros errores de procedimiento que perjudican la concurrencia como puede ser la falta de anuncios todas estas infracciones que han sido detectadas por la comisión europea también

de control económico del gobierno vasco en sus trabajos de control sobre los fondos europeos y ahí lo enlazo con lo que usted decía pérdida no pérdida

y por lo tanto creo que es por eso por lo que el lehendakari en su explicación hablaba de no pérdida final porque ellos cuando detectan

lo tratan de hablar con el departamento de origen y cambian un proceso por otro con el objeto de no perder esa cuantía

tratan de sustituir proyectos con tacha por proyectos sin tacha legal alguna y como esta es una cuestión y ahí venía el origen

considerábamos que quedaba un poco incompleta como esta es una cuestión que no solo afecta al gobierno vasco y no solo hay que poner al gobierno vasco en el foco de atención creemos que hay que señalar también a las diputaciones forales y a los ayuntamientos que también son perceptores de ayudas europeas

público foral o local el que en muchas ocasiones está siendo apercibido y protagonista de estas prácticas por eso en nuestra enmienda incluimos a ayuntamientos y diputaciones que también son poderes adjudicadores en la obligación de cumplir estrictamente la normativa de contratación pública así como también el segundo párrafo de nuestra enmienda que está recogido en la transaccional

pedíamos que en las convocatorias y programas subvencionales del gobierno vasco cuyos beneficiarios sean poderes adjudicadores consignen en su contenido

en las fundaciones en las sociedades públicas y de esta forma abarcamos al máximo de poderes adjudicadores en esta obligación en el seno del gobierno vasco hay que decir que la contratación pública también

y de todo el sector público vasco sino en el conjunto de españa en los últimos cinco años se observa también una mejora espectacular

a la ley de contratos públicos yo creo que es un poco por el cambio de mentalidad y la inversión en la cultura de que evidentemente hay que cumplir con ello y luego también estaba

también se incluye en la enmienda transaccional una apuesta por invertir en investigación innovación e iniciativa empresarial que es una necesidad nueva impuesta por europa

estamos totalmente de acuerdo y además es una obligación que nos viene impuesta por europa

una enmienda transaccional muy completa que abarca todos los aspectos los aspectos del proponente que eran más de tipo

más de orientación de las políticas hacia la innovación y al aprovechamiento a las sinergias dentro del conjunto

al señor damborenea no solo se cumple en este momento la legislación para poder acudir a los fondos estructurales europeos sino que no vamos a renunciar a ellos y

para poder cumplir todas las exigencias que el marco estratégico común esto es de los fondos

los fondos de cohesión o el fondo europeo agrícola de desarrollo rural o el nuevo

van a ir exigiendo vamos a tener que atender a los documentos que ya se están aprobando en el seno de la comisión

ya se presentó el documento propuesta para las disposiciones de todos los fondos del marco estratégico común disposiciones que buscan dentro del presupuesto

en la ejecución de las políticas con una atención especial a los resultados y un mayor recurso a la condicionalidad

como innecesariamente complicadas y difíciles de aplicar es por ello que la comisión buscando maximizar la eficacia de los instrumentos del marco estratégico común busca establecer unas buenas condiciones marco reglamentarias unas buenas condiciones institucionales y de actuación

cada vez una mayor atención a los resultados y al seguimiento

para ello se han presentado una serie de disposiciones comunes a todos los instrumentos estructurales que abarcan el marco estratégico común así como una serie de objetivos temáticos derivados de la estrategia europa dos mil veinte los principios generales para

todos los fondos del mec del marco estratégico común serán la asociación

el cumplimiento de la legislación europea que es aquello que en lo que incidimos en los dos primeras

la transaccional el fomento de la igualdad y el desarrollo sostenible por otra parte el enfoque estratégico también busca maximizar el impacto de las distintas políticas

entre las que está potenciada la investigación al desarrollo tecnológico y la innovación y la mejora del uso de los tics y es justo en estos dos objetivos en los que se introduce como una condición

por cada una de lasregiones o cada uno de los que acuda a estos fondos

cumplir unas condiciones ex ante y después unas ex post que dependerán del rendimiento para la entrega

entrando en detalle las condiciones ex ante que se es allí donde hemos querido incidir en nuestra enmienda y que hemos conseguido

aparece la necesidad de disponer de una estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente que es un concepto que voy a intentar explicar

estas estrategias consisten en una agendas integradas para la transformación territorial que se ocupan de cinco asuntos importantes

y las inversiones buscando priorizar los retos y las necesidades de cada

de cada país resaltan la innovación tecnológica así como la basada en la práctica y aspiran a fomentar la

involucran a los participantes y se basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de monitorización y evaluación estas estrategias surgen al comprobar que la mayoría de las regiones europeas estaban aplicando enfoques o políticas idénticas

esto conducía a una excesiva uniformización que impedía que las ayudas tuviesen una eficacia suficiente en este

distintos informes realizados por distintas investigaciones y grupos investigadores europeos que ven con buenos ojos

el sistema vasco que tenemos en innovación viene remarcando últimamente la necesidad de incidir en una mejor monitorización y evaluación de los resultados así como una mayor y mejor focalización de las políticas que se implementen una previsión sobre la cantidad que se podría obtener de los fondos fue que podría rondar los diez euros por persona y año unos fondos que

para poder acudir a los mismos pero más allá del esfuerzo que requiera poder acudir a los mismo lo realmente importante en nuestra opinión no es

de poder focalizar y monitorizar y evaluar nuestros sistemas de innovación porque

podamos acudir a los fondos europeos sino que es imprescindible en estos momentos

son escasos poder buscar y encontrar la mayor eficacia

por eso creemos que este último punto es importante no solo

moción y estamos también de acuerdo con la transaccional que se ha firmado por lo tanto votaremos a favor de ella nada más gracias eskerrik asko maneiro jauna

los requisitos finales de dichas contrataciones debido por una parte a las diferentes normativas existentes y por otro lado a las dificultades que han tenido y tienen las diferentes instituciones a la hora de implementar los procesos de contratación en relación a los requisitos de los diferentes concursos de contratación en la intervención

ya habían sido subsanadas o estaban en camino de ello el señor damborenea en su iniciativa en el punto primero exige cumplir algo que en teoría ya está subsanado o al menos así lo defendió ya el lehendakari si no lo está y llega a esta cámara la información que así lo atestigüe

y para solucionar ese problema añadido generado por la pérdida de tiempo a la hora de poner los medios necesarios para su solución de la intervención del pleno pasado

que no deja de ser un brindis al sol teniendo en cuenta que eran o parece que eran las administraciones del estado español las que no cumplen con la legislación europea y no quieren cumplir lo cual no quiere decir que las administraciones vascas sí cumplan o cumplan del todo

lo que aquí se exige en esta moción se incumple repetidamente así que hacen falta soluciones también para los contratos de esta administración y no solamente

por lo menos intentemos ser coherentes cuando se hable de contrataciones públicas como decía de aquel debate extraje alguna que otra conclusión que parece que define

en las contrataciones públicas por un lado la falta de compromiso de las instituciones por cumplir las denuncias y las propuestas del tribunal vasco de cuentas

ya que no olvidemos que la dirección del tribunal vasco de cuentas públicas es elegida por esta cámara intentando buscar la independencia del poder ejecutivo pues bien

lo que dicen en uno u otro informe pero sin entrar a valorar la importancia de ese incumplimiento sistemático

es recurrente el problema que se plantea a la hora de gestionar unos fondos que no son recibidos directamente y son conjuntamente gestionados entre el estado español y la comunidad autónoma vasca unos y otros faltan a sus compromisos y a los requisitos a cumplir la solución en este caso es bien sencilla que el gobierno del estado español ceda la representación en europa

lo que facilitará sobremanera la posibilidad de auditoria en dichos fondos los cumplimientos o faltas que se cometan

para terminar diré que en definitiva lo que debería preocupar a esta cámara

que es la única conclusión posible que se debería haber sacado de aquel pleno del día quince de marzo una ley que evite todos los excesos las irregularidades

etcétera etcétera esto sí es un problema real esto sí está siendo demandado por la ciudadanía esto sí por lo menos sería una piedra base que garantizaría el cumplimiento de lo que el tribunal vasco de cuentas denuncia una ley que ponga consecuencias a la mala praxis en la gestión de lo público en definitiva una ley que abra las puertas y las ventanas de las instituciones para que entre luz y aire nuevo

hemen ordezkaritza dugun taldeontzat del fondo de esa ley deberíamos estar discutiendo y no de lo que hacemos ahora que en definitiva no deja de ser una absoluta obviedad

sí brevemente señora presidenta no nos parece ninguna buena solución no recibir los fondos

todos los requisitos y que recibamos esos fondos y por lo tanto vamos a apoyar evidentemente la enmienda de transacción que hemos acordado eskerrik asko